lurralde honetan bizi izan ziren urte ilunak en aquellos tiempos de guerra miles de personas decidieron sobrevivir iniciando un camino incierto hacia otras tierras

sumidos en una larga noche de cuarenta años miles siguieron buscando vidas dignas en otras latitudes primero en américa

algunos de los destinos elegidos por motivos económicos pero también

a barakaldo a eibar o a gasteiz llegaron también miles de personas de todo el estado en busca de más y mejores oportunidades algunas

voluntariamente seguro que si les preguntamos no tenías muchas opciones para poder vivir en los últimos años miles de jóvenes también en euskadi han tenido que emprender viaje para cumplir proyectos de vida sueños profesionales o personales porque aquí la vida no les da las suficientes oportunidades

ha sido una constante en las últimas décadas de nuestra historia

miles de vascas y vascos miles de personas de múltiples procedencias han decidido todas buscar oportunidades en otros lugares y lo siguen y lo seguirán haciendo

y queremos y deseamos que las personas queridas que eligen ese camino lo hagan en las mejores condiciones igual de legítimo eso debería ser al menos que lo elijan las personas que vienen de países bombardeados con las libertades limitadas o con economías precarias porque es legítimo que las personas

y pensamos que también es legítimo que estas idas y vueltas no sean noticia no tendríamos que apelar a la declaración universal de los derechos humanos si no estuviéramos en un contexto de cierre y militarización de fronteras de muros de alambradas de la europa fortaleza un tiempo en el que miles buscan oportunidades porque

y el discurso pero es de seres humanos y de derechos humanos de lo que hoy venimos a hablar

y por lo tanto no se escapa de esta realidad las migraciones el refugio y en especial hoy las personas en tránsito

agenda vasca porque la agenda vasca desde las instituciones la tenemos que abordar y por lo tanto esta temática la tenemos que asumir con responsabilidad

a mejorar la situación que nos toca en casa no en madrid no en europa aquí

y aun sabiendo que hacen falta soluciones integrales hoy proponemos una parte soluciones multidimensional pero por un motivo u otro dos grupos no han registrado opinión y los partidos que sustentan al gobierno dicen que no es de su competencia y se ponen a hablar de otra cosa algo que no está mal pero que desde luego no es de lo que queríamos hablar porque unas por otras nuestra casa sigue sin barrer y aquí no pasa nada

o peor aún normalizamos situaciones de una profunda injusticia hace ya más de un año que se viene sucediendo un aumento de personas en tránsito asentadas

pese a los desalojos reiterados ahí siguen porque como ya hemos dicho en más de una ocasión

personas que pasan por euskadi camino al reino unido y que por razones que desde luego escapan de sus manos

se juegan la vida se está generando instalando y lo que es peor naturalizando una situación hartamente compleja una situación dolorosa y peligrosa para las propias personas en tránsito pero no solo para ellas también para el conjunto de euskadi y aquí no hay varita mágica eso lo sabemos

es cierto que algunas de las causas provienen de decisiones tomadas en otros lugares o por instituciones y poderes ajenos a esta casa y desde luego al gobierno pero desde nuestro grupo proponemos soluciones que aunque hoy parezcan parciales o pequeñas nos permiten caminar a lo que sí podemos hacer para empezar y repitiendo algo que ya nos hemos comprometidos en reiteradas ocasiones nuestro grupo apuesta por que se cumpla con la transferencia de la competencia de la sección de los puertos queremos esta gestión desde aquí y así lo hemos manifestado en diferentes ocasiones

en el mientras tanto y con las competencias que ya tenemos en la mano se pueden impulsar más medidas y se puede hacer incidencia política en otros ámbitos y niveles para mejorar

señor lehendakari se debe ustedes señoras y señores del gobierno

es por eso que ante el debate que iniciamos ahora lo que nos parece a elkarrekin podemos que falta no son competencias sino voluntad política compromiso real compromiso de no seguir echando balones fuera porque dentro de la dificultad competencial que opera en torno al puerto de bilbao que es lo primero que reconocemos y tratando de hacer un mapeo de todo lo que confluye en esta situación

por un lado a nivel estatal por otro lado al local y al autonómico porque en esta proposición que se trabaja hoy aquí

todos esos niveles pero estos no pueden estar unos sobre otros tienen que ir

tienen un contacto frecuente con las personas en tránsito y a menudo en situaciones digamos de gran complejidad para todas las partes y aquí a hay tarea de las instituciones vascas

que corresponde tenemos claro que la seguridad no es el único actor que opera en esta situación uno de los ejes que nos preocupan un eje que es fundamental porque la seguridad del puerto es un actor clave en esta situación insisto no el único pero sí un actor clave

y las y los vecinos y sin duda nos preocupa la situación que están teniendo que afrontan profesionales que no necesariamente están formados

y al gobierno le preocupa la seguridad la de los ferris las mercancías y las empresas en conclusión y tratando de buscar puntos en común a todas nos preocupa la seguridad la de las infraestructuras críticas y también la de las personas aunque pareciera que a

ante esta preocupación tenemos distintos caminos que tomar el de la autoridad portuaria de bilbao construyendo el muro de la vergüenza

para tareas de control y vigilancia aumentando la presencia de seguridad privada u otro otro como dotar de más y mejor seguridad de más y mejor conocimiento

y no tiene herramientas para hacerlo condiciones que van a mejorar sin duda o que podrían mejorar si se llegase a un acuerdo la seguridad del conjunto de los seres humanos que está en torno a esta situación les informo para quienes no manejen habitualmente estos temas que el personal adscrito al servicio de policía portuaria

sí que tiene un rol fundamental en el control y mantenimiento de la seguridad del recinto portuario y también tiene un deber de colaboración a requerimiento de estas fuerzas y cuerpos de seguridad

la plantilla de la policía portuaria en dos mil diecisiete estaba integrada por ciento cinco personas ciento cinco personas sin formación específica en derechos humanos o en trato con nacionalidades diversas pero no solo eso a través de los medios y de comparecencias en ocasiones en las que hemos podido abordar esto

que en este tema intervienen fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pero también

en este mientras tanto en el que estamos hay una amplia diversidad y pluralidad de trabajadoras y trabajadores en tareas de seguridad nosotras no queremos volver a poner esta especie de viñeta en la que la gente es derivada de un cuerpo al otro de seguridad lo que queremos es que las personas sean tratadas

llevamos teniendo un asentamiento de personas en tránsito un año o año y medio y ante esa realidad entendemos que es fundamental que se trabajen nuevos conocimientos competencias en todas las personas involucradas nuevas herramientas para que las y los profesionales que no necesariamente tienen porqué saber puedan enfrentarse a esta situación es por ello que hoy traíamos esta propuesta una propuesta para que sean estos agentes quienes adquieran o actualicen su formación en materia de derechos humanos porque

debe ser abordada con seguridad para todas las partes para las mercancías para las personas y también para las profesionales situaciones

los derechos de las mercancías los polizones situaciones en que la formación y la información son clave se necesitan garantías

para las que intervienen en la seguridad y para las que tienen que ser tratadas con seguridad todas necesitan contar con un marco claro y con una garantía de que su actuación es la correcta para ello planteamos soluciones que van más allá de los muros y del aumento simple de profesionales ponemos sobre la mesa

plantear nuevas formaciones actualizar las existentes complementar las existentes elaborar un diagnóstico de necesidades de estos cuerpos y fuerzas y personal de seguridad

porque en materia de derechos humanos que no se nos olvide competencia tenemos todas que se impulse la realización de una formación específica porque no existe para la plantilla de la policía portuaria de la policía municipal que opera en las inmediaciones del puerto

con el gobierno estatal para las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y todo esto

no permite más dilaciones además y porque sabemos que no partimos de la nada entendemos que se ha de crear un marco de trabajo común con el observatorio de los derechos humanos que está impulsando el gobierno en colaboración con la cruz roja podríamos haber alcanzado un acuerdo podríamos haberlo enfocado de otro modo podríamos haber negociado

hoy nos quedamos solas pero con la cabeza bien alta porque digan ustedes lo que digan este tema no puede salir de la agenda vasca es una agenda

pero es agenda porque afecta a la talla moral de esta tierra

porque tenemos responsabilidad oportunidad y posibilidad de hacerlo mejor y ustedes están mirando a otro lado

desde el lugar de que tenemos que encontrar la tarea de todas aunar esfuerzos es sin duda la mejor solución para las personas que se ven afectadas por esta situación para las que están en tránsito y para las que están teniendo que improvisar día a día en su profesión ante la desidia de quien no les da herramientas

múltiples sistemas de cooperación para conseguir llegar a acuerdos que conlleven una efectiva formación policial complementaria adecuada a la situación que estamos abordando hoy si consideran que traerlo aquí no era lo que teníamos que hacer tendrían que haber planteado otro tipo de enmienda o tendríamos que haber hablado en otro tipo de espacios pero no lo han hecho mirar a otro lado y eso para nosotras es no tener voluntad política para que este tema sea una prioridad gaur ezinezkoa izan da ere

gracias señora presidenta buenas tardes a todas y a todos

gruesas pero con palabras gruesas tampoco debería de haberse empezado

hay cuestiones del gobierno de las instituciones vascas de esta y otras

establecer otro tipo de prioridades pero yo creo que esta precisamente no es una de ellas no es una de ellas y además la proponente o la persona que ha hablado en nombre del grupo

se podía haber hecho otra enmienda sí se podía haber hecho otra enmienda pero la cuestión es que la enmienda presentada responde a los criterios con los que

una cuestión que además no es la primera vez que lo décimos porque no es la primera vez que se ha debatido este tema y no es la primera vez que en el gobierno vasco al menos en el ámbito

que es el de los derechos humanos lo ha tratado hemos tenido lo conoce la señora

antes de las vacaciones de semana santa digo porque tengo

de coordinar ese grupo intentar otra reunión para coordinar más la información no fue posible por la acumulación de tareas de trabajo de las distintas parlamentarias que forman parte de la ponencia bueno y un parlamentario el señor barrio

puede decirse que no se actúa conforme a las políticas que el grupo

pero no se puede decir ni que no se ha tenido información ni que para el gobierno vasco actual como otros anteriores no se ha hecho

desde el principio desde el respeto a los derechos humanos hablamos de este colectivo en concreto porque vamos a ir centrando un poco el debate

son mayoritariamente personas en tránsito no son migrantes que quieran desarrollar su vida e integrarse en la sociedad vasca los que se puede plantear otra perspectiva de atención

de lo posible que todos los poderes públicos cuya competencia sea de nuestro país

los derechos básicos en este paso por nuestro país sea transitorio sea definitivo

y se hace porque se ha hecho siempre porque hasta cuando se les privó

en el resto de españa se mantuvo aquí porque se hace también en la educación porque se intenta también hacer en la protección social y porque incluso tenemos un plan de derechos humanos y convivencia que no lo tienen otras comunidades autónomas o no lo tiene el estado para responder de manera integral a estas actuaciones ese plan

hace referencia incluso específica a cómo afecta la formación en derechos humanos el principio de humanidad de solidaridad y de responsabilidad con respecto a la ertzaintza y al resto de poderes públicos que tengan que intervenir y yo sé que usted comparte esos principios

pormenorizadamente cuál era la situación cuál eran las propuestas que íbamos a actuar que íbamos a responder y en la medida de lo posible además tomamos nota del hecho de que podía haber determinados movimientos ya delictivos de tramas

poner especial acento yo he mirado un poco cuál es la formación los cursos de formación no llevo ese ámbito pero he mirado los cursos de formación que se dan en la ertzaintza supongo que en las otras fuerzas y cuerpos de seguridad

lo mismo yo también creo efectivamente que debe de haber esa formación y que tiene que ser coordinada

tanto territoriales dentro de nuestro país como a nivel estatal en las que pueden poner en común esa actuación conjunta de todas las policías esa formación

de odio frente a la trata frente a la discriminación que puede ser informada de la misma manera

creemos que el tema de la seguridad no se afronta solo con policía

todas las intervinientes en el tema de inmigración políticas migratorias y refugiados en este parlamento

hemos compartido eso mayoritariamente que las políticas de seguridad no van a resolver únicamente de seguridad el problema de las políticas migratorias

o proposiciones no de ley con que las mismas atiendan a garantizar los derechos humanos yo no me voy a desdecir de ellas pero tampoco voy a hacer que se desdiga el grupo proponente porque sé que las comparte se están atendiendo las necesidades y los derechos básicos de las personas en relación

mi grupo con ocasión de otro debate que trajo también el grupo de elkarrekin podemos más relacionado con la infraestructura del puerto ya pudo

su opinión del muro pero no es la decisión mía ni de este parlamento construir un muro o no dentro del puerto de bilbao

lo que compete a este parlamento y al gobierno al que controla este parlamento es que las políticas de

dentro de ese ámbito respondan a los principios de derechos humanos que están en el acuerdo de gobierno

otra cosa es que podamos contralar si se hacen mejor o peor y lo mismo en un plan de convivencia

hemos formado parte yo no voy a cuestionar en ningún caso que la propuesta de elkarrekin podemos pueda mejorar esas actuaciones para garantizar los derechos básicos de las personas en tránsito en la actuación de los poderes públicos no creo que puede formar parte a través de su planteamiento coordinado u organizado entre las diferentes policías actuantes

dentro de ese ámbito lo que yo opino modestamente

que es usted a la que me dirijo eh es que esto se pueda hacer de una manera integral

debatido en relación a este tema porque dentro de nada tendremos una proposición también no de ley presentada por el grupo podemos que tiene idéntica denominación que esta otra justificación y otras medidas nosotros podemos entender que se hubiera

o presentado como una actuación conjunta pero por el hecho de que podemos elkarrekin podemos lo presente de esta manera yo en ningún caso me atrevería a cuestionar

del grupo de elkarrekin podemos con los derechos humanos en las políticas públicas su exigencia su control y allí donde lo realizan su ejecución nunca otra cosa entonces no se puede cuestionar lo mismo porque se presente una enmienda u otra

insisto yo no estoy en el gobierno vasco formo parte de uno de los grupos que apoya y en otras cuestiones evaluable en función de la ideología política cómo se responde o cómo no se responde a esta cuestión en esta yo

que hemos tenido una información muy detallada que se está haciendo un esfuerzo

coordine el respeto la garantía para esas personas de los derechos básicos y desde luego en colaborar también con las otras

sobre cómo se cumplen los derechos humanos

sobre las decisiones que allí se toman pero cada uno está en el lugar que está tiene la información que tiene y conoce

sus gobiernos y la oposición y yo creo que de verdad

la propuesta puede estar bien planteada para nosotros la respuesta es más integral pero desde luego los juicios de valor en ningún caso a mí se ocurriría de verdad jamás hacerlo

en este caso y con respecto a ese tema ni a ninguno de los grupos de la cámara gracias

debemos tener en cuenta que se trata de una realidad de especial sensibilidad y al mismo tiempo debemos ser sinceros y responsables en lo que décimos con el objetivo firme de garantizar la dignidad la seguridad los derechos y lo deberes de todas y cada una de las personas e instituciones que participan en la misma

vertiente por un lado están las obligaciones legales que asisten al puerto de bilbao a través de la diferente legislación en vigor y también está la garantía de los derechos humanos de las personas de todas las personas

kontrolatzea eskatzen dute del mismo modo debemos tener en cuenta las limitaciones

cuerpos de seguridad cada uno de ellos con sus propias competencias policía portuaria adscrita a la autoridad portuaria seguridad privada contratada por el propio puerto

es por eso por lo que se nos hace difícil pensar que sea factible lo que elkarrekin podemos solicitaba en su propuesta ya que entrar desde el gobierno vasco

de seguridad sobre los cuales no tenemos competencia que modifiquen sus planes de formación o que los adecúen sería cuando menos algo difícil o complicado de llevar a cabo además no debemos olvidar que tanto ertzaintza como policías

protección civil o alguaciles reciben formación continua y actualizada a los retos que va exigiendo la sociedad esto se realiza a través de arkaute y el plan formativo y el plan de actividades

anuales que se van actualizando de forma anual por dar algunos ejemplos en este mismo año dos mil dieciocho un total de ochenta y cuatro agentes

en el curso actuación antiintrusiones comunicación verbo corporal

un curso sobre todo centrado en esa policía de cercanía que reclamamos tantas veces y desde tantas instancias también se trabajan temas de interculturalidad

violencia de género procedimientos policiales talleres de discriminación y delitos de odio etcétera talleres por cierto y cursos que no solo se imparten para la ertzaintza

otros colectivos de seguridad después también tenemos la situación a nivel interior del puerto donde no debemos olvidar la funcionalidad y el objetivo que tiene una

no es otra que la transferencia de pasajeros y mercancías

economía rapidez y también seguridad es por ello que la seguridad en el transporte de pasajeros y mercancías en el recinto portuario

además de una expresa exigencia legal recayendo en las propias autoridades portuarias su cumplimiento y también en las propias fuerzas de seguridad y cuerpos que están presentes en el propio

desde una perspectiva de atención integral y personalizada a cada una de ellas por ello desde hace tiempo se vienen realizando una serie de acciones en las cuales está participando el gobierno vasco además de otras

un trabajo previo realizado sino más bien al contrario desde hace meses se viene trabajando

por recordar algunas de ellas se han mantenido diversas reuniones tanto bilaterales como institucionales y sociales a fin de poner en común tanto informaciones como propuestas que se puedan llevar a cabo

entre las cuales están participando instituciones agentes sociales y otros colectivos algo además en lo que ahondamos en la enmienda a la totalidad presentada con el grupo socialista

en este asunto del mismo modo también se constituyó hace unos meses una comisión interinstitucional en la cual está representado tanto gobierno vasco diputación foral de bizkaia ayuntamientos que están implicados es decir abanto zierbena

y otros colectivos y en ellos están trabajando sobre cinco pilares básicos que son fundamentales en este tema

y se reitera una vez más también la asistencia humanitaria informando y asesorando a todas las personas que llegan a euskadi de las opciones legales que les asisten y también

a nivel social a las que pueden acogerse la prevención que también es fundamental considerando el alto riesgo que pueden correr cualquier persona que entre en el puerto de bilbao la seguridad y por supuesto la convivencia con vecinos y vecinas del entorno

una oferta del catálogo de servicios sociales de los diferentes municipios que están implicados o posibilidades de albergue para que estas personas puedan ir dando pasos en sus proyectos de vida e ir conformando el proyecto de vida deseado son fundamentales y es que además

bermatuz euskadi es un pueblo responsable y también es un pueblo solidario y lo ha sido siempre y como tal ofrece a todas las personas por igual su ayuda y también de forma comprometida sobretodo también realista y responsable en definitiva y teniendo en cuenta que el objetivo de la proposición no de ley de hoy era garantizar los derechos humanos en el puerto de bilbao desde nuestro grupo

en la enmienda a la totalidad suscrita con el grupo socialista en primer lugar creemos que hay que seguir fomentando la coordinación interinstitucional

hacer un seguimiento del puerto y de las diferentes situaciones que se puedan dar en el mismo tanto dentro como fuera del mismo y en el que participen instituciones colectivos agentes

en nuestra enmienda a la totalidad hay que trabajar bajo el principio de responsabilidad garantizando

trabajadores y trabajadoras del puerto de bilbao y finalmente y hoy más importante que nunca

atención personalizada y alternativas a todas las personas garantizando los derechos humanos de los mismos y la cobertura de sus necesidades humanas más básicas

buenas tardes a todos la verdad es que lo primero que tengo que decir en esta intervención hablando sobre derechos humanos en el puerto de bilbao

si este grupo está legitimado para hablar de derechos humanos después de los insultos que hemos recibido esta mañana que no voy a decir por quién porque si no es capaz de pedir la palabra por alusiones e incluso igual se la dan e intervienen de manera extraordinaria

no lo estoy yo y a lo mejor no lo está nadie de mi grupo verdad pero bueno como somos un grupo elegido por los ciudadanos vascos que son los que nos han votado

en la defensa de los derechos humanos pues vamos a intervenir en este

efectivamente y como se ha dicho aquí en las inmediaciones del puerto de bilbao en terrenos de titularidad

existen asentamientos de extranjeros que penetran en el mismo con la intención de abordar como polizones alguno de los buques que tienen por destino

nacionalidades el noventa y cinco por ciento de estas personas tienen nacionalidad albanesa y son

sin que se perciba presencia de mujeres ancianos o niños con relación a problemas de exclusión social

por parte de la portavoz del partido socialista se ha dicho no parece que estos problemas vayan a existir porque el objetivo no es asentarse en españa y en euskadi

abordar un buque con dirección a gran bretaña se ha dicho aquí se dijo cuando se trató este punto en un pleno anterior se han realizado gestiones

esta cuestión y se están buscando alternativas para que las condiciones de vida sean adecuadas y para la protección integral de esas personas y sus derechos

a través de esa coordinación interinstitucional condiciones dignas atención personal y todo ello desde una perspectiva de atención integral pero esta situación

se viene detectando esta incursión irregular de ciudadanos fundamentalmente como digo albaneses en el puerto de bilbao con la intención de pasar al reino unido sin los requisitos necesarios en vigor

problemática social ya en mayo del año dos mil catorce se mantuvo una reunión entre la autoridad portuaria de bilbao que gestiona dicho recinto portuario y distintos actores

de solucionar estos hechos que ponen no olvidemos en peligro manifiesto la integridad física e incluso la vida de estas personas que intentan acceder y viajar de forma indebida

realizando esa estrategia compartida de trabajo en noviembre de dos mil catorce se produjo una reunión entre las autoridades de inmigración de reino unido el director adjunto de la compañía

antes mencionados donde se trató distintos aspectos

portuaria y otros actores con distintos cometidos en el puerto y en dichos

de este fenómeno y decir que se ha convocado de manera extraordinaria dos comités consultivos monográficos como se ha dicho aquí con arreglo a nuestro ordenamiento jurídico constitucional distintas competencias

los puertos según nuestra constitución son competencia estatal

de la comunidad autónoma vasca de la ertzaintza por lo tanto como

realizando esa labor diaria bajo las distintas competencias que tienen asignadas se habla aquí de la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pues bien con relación

del estado que tienen encomendado en el control de entradas y salidas del territorio nacional por el puerto de bilbao

sobre extranjería estas funciones están realizadas por funcionarios policiales especializados y con amplia experiencia en materia de extranjería

por parte de otros operadores de seguridad hay que decir para que quede claro que los albaneses no necesitan visado para entrar en territorio schengen por lo tanto aquí están de manera legal

prorrogables por otros noventa su estancia de bien irregular a partir del momento en el que se evidencia que su propósito no es estar en euskadi sino que su propósito

ahí es cuando se le aplican las medidas de extranjería y en la aplicación de esas medidas de extranjería no se han producido

por las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ya que como decía los funcionarios actuantes disponen de formación en derechos humanos que reciben todos los funcionarios

con una formación específica en extranjería y con una acreditada experiencia en el desarrollo de su labor están plenamente capacitados para desempeñar las funciones que la legislación les atribuye sin perjuicio del lugar en el que se hayan producido

en el caso de las personas en tránsito a las que se refería la proposición no de ley como digo

la misión de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la policía nacional y guardia civil es el control

la posible victimización de esas personas por parte de las redes y mafias que actúan en este ámbito

que vienen a desarrollar los procedimientos establecidos en la legislación y los planes de protección a las víctimas planes

como se ha dicho aquí y con organizaciones no gubernamentales para garantizar la adecuada asistencia a estas personas

y con departamentos institucionales tales como acción social de la diputación foral de bizkaia o la concejalía de acción social del ayuntamiento de santurtzi y por supuesto colaboran diariamente

en un pleno anterior con relación a la formación en derechos humanos se ha hablado aquí tanto la ertzaintza como

formativos que existen en arkaute y con relación al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado también en el ley orgánica dos barra ochenta y seis aparece recogido está formación que por supuesto lleva implícito el absoluto respeto a los derechos individuales a tenor de esta regulación estatal los planes formativos están diseñados

para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y que incorporan entre sus contenidos la formación en materia de protección de derechos humanos así como las consecuencias que en el ámbito penal o disciplinario pudieran derivarse en los casos de incumplimiento por agentes policiales de esas garantías que impone la legislación para salvaguarda de estos derechos humanos y dentro de la formación impartida en esta materia

el conocimiento y el deber de colaboración con instituciones y entidades nacionales e internacionales que periódicamente examinan el cumplimiento en nuestro país de la protección que las autoridades vienen obligadas a dar a estas personas

que cuentan con el apoyo de los distintos municipios en los que se desarrolla en nuestro caso

funcionarios policiales militares así como distintos miembros de la policía portuaria autoridad portuaria y personal de puertos del estado algunos como ponentes

ilegal entre los requisitos para acceder a la realización de dichos seminarios está el de haber superado

sobre derechos humanos y ética policial y entre las materias que se imparten durante el mismo se encuentra el seminario de derecho internacional humanitario por lo tanto la formación que aquí se solicita existe la colaboración interinstitucional que se pide

que genera tipos humanos originales poco respetuosos con las reglas y la sacrosanta autoridad si este tópico fuera

anatol maritxu entró a trabajar

con gran escándalo pues se consideraba que no constituía

española y francesa y muchos deseos de aventura y acción que no se saciaban con el papeleo de la oficina ni con asuntillos de contrabando principal actividad del irun de la época cuando estalló la guerra civil

se trasladó al otro lado del bidasoa en el verano de mil novecientos cuarenta los alemanes confiscaron la planta baja de su vivienda

se alojaron allí la resistencia le ofreció colaborar en tareas informativas y de paso de fugitivas y ella dijo sin pensarlo dos veces su temperamento inquieto encontró por fin acomodo en las actividades clandestinas hacía de todo un poco

el horario y movimientos de las patrullas alemanas trasladaba a los fugitivos abastecía a los aviadores derribados

buscaba alojamientos éramos un grupo de aventureros de personas decididas así definía retrospectivamente su actividad pasó por la comisaria de la gestapo en baiona y por la prisión de biarritz

hala ere baloreen atalari begiratuko bagenio powerpoint horretan bertan compromiso con las personas y responsabilidad

una enmienda a la tristemente famosa ley mordaza que incluyese la expulsión a extranjeros que pongan en riesgo instalaciones básicas como los puertos hacia ahí es hacia donde queremos transitar y mirar esos son los pasos que queremos dar o alimentamos discursos xenófobos y alarmistas

que se está dando en el puerto de bilbao vuelvo a repetirlo esto es una propuesta un intento otro grano de arena lo intentaremos una

espacios en donde primen el respeto a las personas los derechos humanos y la solidaridad internacional

behar dituzte y solo quiero acabar mencionando a aquellas personas que enfrente a estas situaciones han decidido dar el paso como en tiempo lo hizo maritxu anatol

que fue encarcelada esas personas que están siendo encarceladas quienes están pendientes de juicio como open arms ongi etorri errefuxiatuak plataforma vosotras sois el referente

la prioridad de la guardia civil y de la policía nacional es la detención

las de las entidades sociales intervinientes la asistencia humanitaria pero

cuando en algún momento suceda porque sucederá un incidente

si cada cual miramos a esto de una manera parcial difícil será encontrar soluciones integrales señora romero no se enfade no he cuestionado su compromiso personal cada cual está donde está lo que sí he cuestionado es que miren a otro lado porque yo

y luego podemos seguir hablando lo que quiera porque me consta que su compromiso con los derechos humanos no es cuestionable y no estoy hablando de eso yo no he cuestionado en ningún momento el compromiso lo que he cuestionado es que

y ustedes hablan de otra y no pasa nada si nos vamos a abstener a la proposición de los partidos que sustentan al gobierno porque no es una proposición contra la que tengamos nada pero no es lo que veníamos a abordar hoy no pongo en cuestión su compromiso pero no me puede usted negar tampoco

esto es un tema nuevo y por lo tanto habrá que buscar soluciones nuevas esto

la señora etxebarrieta un granito de arena no pretende

mano a donde haga falta hablemos del plan de derechos humanos hablemos de la división artificial que hace este gobierno entre personas migrantes y personas refugiadas hablemos de por qué presentar diferentes propuestas porque si lo presentamos todo junto porque presentamos mucho y si lo presentamos separado porque va separado entonces bueno lo que vamos a seguir haciendo es lo que consideremos mejor todas no tengo duda de que usted también y no tengo duda de que recorreremos camino juntas señor álvarez

usted visto yo estoy bastante pendiente y preguntando constantemente hay mucha información de la que también de la que usted ha dado que yo ya conocía

para muestra un botón ochenta y cuatro agentes en uno de los cursos que ha mencionado ciento cuarenta en otro más de mil en las actuaciones antiyihadistas ahí también se ven las voluntades

existe desde luego desde hace más de un año una situación y las soluciones que parece que se ponen sobre la mesa yo como no estoy en el gobierno

desde luego lo que parece que se pone constantemente sobre la mesa son reuniones reuniones que según respuesta son a título informativo capacidad impresionante

están haciendo y desde nuestra óptica lo que están haciendo hoy es decir que no a reforzar y a dar seguridad a quienes están trabajando con situaciones que no tienen porqué saber abordar porque no tienen porqué tener herramientas para ello señora llanos habla de asentamientos habla de

no le quitemos la condición de seres humanos hablemos de personas porque eso también

la realidad no es una situación nueva claro que no desde dos mil catorce y desde mucho antes polizones ha habido y seguirá habiendo por eso exigimos vías legales y seguras y en eso su partido y el gobierno del estado español tiene mucho para decir señora llanos policía especializada sí pero es

cuerpos o grupos de personas que no son cuerpos de seguridad que intervienen en todo esto de acuerdo es una sexta parte así que no soluciona

insistimos en él mientras tanto seguimos sin hablar de lo que realmente importa seguimos sin hablar del tema simplemente

quiero aprovechar este turno de réplica para pedirles que me respondan a una pregunta

pero cuál es el problema de evaluar qué formación existe y adaptarla a una situación que proteja a las personas en tránsito que sí es un fenómeno nuevo en euskadi

cuál es el problema han preguntado ustedes de verdad a las personas que están desempeñando este trabajo

o esta es la formación como la que se supone que tienen los bomberos que como

mucho por hacer lo primero que esto no desaparezca de la agenda si con eso hoy hemos conseguido aunque sea

el de ambos es el que he manifestado aquí y he dado mi opinión en nombre del partido socialista al que represento hasta que me echen no creo que me echen pero vamos desde luego

el compromiso con los derechos humanos y el compromiso que cree que tiene también el gobierno vasco y he dicho que los partidos de esta cámara porque lo hemos compartido en este aspecto

en esa propia reunión por lo tanto ni una duda de ello ni una duda además respecto a las lecciones es que es muy fácil dar lecciones en esto

porque entiendo que en el ejercicio del gobierno que haya hecho el partido socialistas habrá cometido

cometido también el gobierno vasco ahora que podemos ayudar desde la colaboración porque sabemos todas las instituciones que tienen competencias a que mejore porque sabemos porque lo sabemos que la señora mónica hernando

que dependían de las competencias del gobierno vasco y las instituciones forales en la medida de lo posible coordinándolas coordinándolas y atendiéndolas que estaban ofreciendo alojamiento que estaban ofreciendo

que incluso se les planteó el órgano de colaboración que saben que hay un órgano de colaboración que se está trabajando conjuntamente

por supuesto que no que se ha atendido a las propuestas de los grupos que hemos hecho en la cámara en el plan de convivencia

que debe de haber más reuniones del intergrupo sí cuando podamos asistir todas cuando podamos asistir todas cuando se convoquen y podamos asistir todas entonces las haremos y podrá venir como se ha ofrecido

por lo tanto yo creo que la cuestión de hacer de la política de los derechos humanos

al otro en este parlamento conmigo no lo van a encontrar

no lo van a encontrar porque además estamos hablando de propuestas integrales esto no es una propuesta integral es una propuesta parcia positiva sí sí que es positiva

debe haber más formación claro que a lo mejor la formación de la guardia civil es mejor o peor no lo sé no la conozco la de la ertzaintza es la que me han comentado a lo mejor no me la han comentado tan bien como al señor álvarez pero me la han comentado

pero usted y yo sabemos que son soluciones parciales hemos compartido que las soluciones son integrales tres de los principios que ha mencionado el señor

comparte porque usted conoce muchísimo mejor que yo porque se dedica a eso y tiene un conocimiento profesional mejor

y que se está intentando hacer y que se hace mucho mejor que en el resto del estado en muchos sitios por lo tanto lo que digo es que hay que tener

sino también de nosotros cuando hablamos y nos pronunciamos sobre un asunto porque habrá cuestiones en las que nos podremos echar los trastos a la cabeza pero en este país yo creo que ya en el tema de los derechos humanos

señora guanche yo no creo que sea mirar hacia otro lado comprometerse a ofrecer atención personalizada a todas las personas tampoco creo que lo sea ofrecer los servicios sociales de base que se están ofreciendo tampoco que se adapte la formación de la ertzaintza a los retos

la sociedad en el avance de esta situación y además estoy seguro que el departamento de seguridad lo va a tener en cuenta a la hora de realizar los cursos de formación para

cuerpos de protección civil etcétera le insisto creo que tenemos que trabajar sobre los tres puntos

tres puntos fundamentales además le recuerdo que una proposición muy parecida la ha trasladado su grupo al congreso de los diputados donde quizás

sentido por la competencia completa de puertos y también porque allí tienen la competencia de seguridad en materia de guardia civil policía nacional etcétera y por lo tanto poco más eskerrik asko

este asunto ya se abordó con otra óptica diferente pero se abordó

en un pleno anterior la verdad es que dicen que nosotros no nos pronunciamos

si yo no le digo que haya nada de malo en su iniciativa

es que mire ustedes en esta cámara a veces pecan

porque parece que antes de ustedes no había nada y que si ustedes no proponen algo no se ha hecho nada y no se hace nada y no hay nada y es que ya se está haciendo mejor peor probablemente se pueda completar pero se hacen cosas se hacen cosas y mire yo no voy a poner en duda en ningún caso ni la de la señora romero ni la del señor álvarez ni su

de los derechos humanos pero también le digo una cosa no tienen el monopolio es que hay determinadas fuerzas políticas que parece que tienen el monopolio en la defensa de los derechos humanos y no es así y no es así lo que pasa es que en ocasiones hay responsabilidades de gobierno que ustedes no las tienen y las leyes hay que cumplirlas cuando no gustan se pueden cambiar

que la policía nacional y la guardia civil su objetivo

su objetivo es el cumplimiento de la ley lo que sucede es que aquel que infrinja la ley en ocasiones es detenido es diferente es distinto y yo le diré una cosa yo claro que hablo de seres humanos pero lo que le he dicho lo que he hecho cuando me ha referido a quiénes son fundamentalmente las personas que están en ese recinto

es contextualizar la situación claro que son seres humanos claro por supuesto pero yo le estoy diciendo qué son y además no son refugiados ni siquiera son migrantes son personas en tránsito porque su objetivo

no es quedarse en euskadi independientemente de que es verdad que las autoridades vascas tengamos que dar una respuesta en coordinación con el resto de las autoridades españolas para en el periodo de tiempo que estén aquí

un respeto una vida digna unas condiciones dignas y evidentemente darles una solución integral

a una de estas personas una plaza en un albergue y no quiso ir por qué porque estaba muy lejos del puerto de bilbao

su objetivo es encontrar la situación para acceder al barco como polizón no quería alejarse del puerto de bilbao

eso es contextualizar la situación y decir qué es ante lo que nos encontramos y qué respuestas tenemos que dar que probablemente sea mejorables pero que se están haciendo cosas que se hacen cosas que hay planes formativos

y de las policías locales y le he dicho que al resto de autoridades que participan en la seguridad y en la protección

que un día habrá una desgracia evidentemente esperemos que no la haya pero precisamente muchas de las cuestiones que se están llevando a cabo es para evitar eso para evitar que no tengamos que ver una desgracia de una persona asaltando un barco y que tenga una

y no lo hemos negado sabemos que no es una propuesta integral hay otras propuestas encima de la mesa que de hecho trabajamos activamente en ellas y seguiremos trabajando pero bueno supongo

señora guanche pero la necesidad de traer

muy especial y muy específica justamente porque no se está diciendo que no se estén haciendo este tipo de formaciones y que no existen este tipo de formaciones sino que hoy en día se está dando una situación muy especial que necesita de formación específica en torno a ello nada más y nada menos

sí gracias señora presidenta buenas tardes señor lehendakari consejeras señorías el veinticinco de septiembre de dos mil quince se aprobó en la cumbre de desarrollo

esto supone avanzar y renovar el compromiso que se adquirió por la comunidad internacional en el año dos mil cuando se suscribió la declaración del milenio

objetivos milenio y como compromiso fundamental combatir la pobreza en sus diferentes dimensiones los diecisiete

metas que los integran conforman la agenda dos mil treinta

social y ambiental un plan de acción en favor de las personas el planeta y la prosperidad y también pretenden fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia la gestión de la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible exige en alianzas solo hace falta echar un vistazo a los diecisiete objetivos para entender que ningún gobierno institución empresa u organización podrá ser eficaz si trabaja en solitario se necesitan alianzas transversales

y sociedad civil en definitiva coordinar políticas públicas con estrategias privadas cooperar en la búsqueda de soluciones innovadoras

y consensuar entre todos los actores las prioridades financiación y capacidades necesarias para cada meta e indicador en esto estamos y tratando de establecer herramientas para divulgar hacer partícipe a la sociedad en general

objetivos objetivos que se pueden estructurar en tres grupos los que se centran en la lucha contra la pobreza en todas sus formas los relacionados con los compromisos

se puede destacar algunas claves que marcan la agenda dos mil treinta el desarrollo humano sostenible debe ser igual para todas las personas independientemente donde vivan el desarrollo sostenible hay que abordarlo desde la vertiente social

fijando objetivos y metas concretas es importante priorizar medidas para erradicar cualquier tipo de desigualdad dentro de los países y entre estos haciendo hincapié en los principios de igualdad y no discriminación

no son jurídicamente obligatorios pero se consideran de aplicación universal y españa se ha comprometido junto con la comunidad internacional a adoptar estos objetivos como propios y establecer un marco de compromiso coordinación divulgación y rendición de cuentas ya en julio de este año españa voluntariamente presentará un informe de autoevaluación del trabajo que se está realizando también esta comunidad autónoma aportará

aquellas acciones que hasta ahora se están realizando este informe como digo se presentará ante el foro político de alto nivel de naciones unidas

del congreso está siendo protagonista de gestionar la implantación de la agenda dos mil treinta de los objetivos de desarrollo sostenible y en noviembre de dos mil diecisiete todos los portavoces de los grupos políticos del congreso

fijan una orientación a la política del gobierno en la definición de la estrategia nacional para el cumplimiento de la agenda dos mil treinta donde establecen las líneas generales

para el cumplimiento de esta agenda dos mil treinta y donde nos ponen deberes nos ponen deberes a todos y también en la coordinación territorial nos dicen que hay que impulsar mediante los mecanismos de cooperación existentes la elaboración por la comunidades autónomas

de desarrollo sostenible deberán coordinarse adecuadamente con la comisión interterritorial de cooperación para el desarrollo para promover acciones

reducir la fragmentación y costes administrativos y dotar las políticas y la gestión de la cooperación descentralizada de mayor coherencia urge un cumplimiento a la mayor celeridad de esta exigencia básica en un estado descentralizado

del congreso de los diputados portavoces de nuestros grupos no puede olvidarse tampoco a este respecto la adecuada integración con las competencias de las entidades locales

las más próximas a la ciudadanía mediante la adecuada coordinación de las mismas en la federación estatal de municipios y provincias el secretario general de naciones unidad dijo en el año dos mil doce que nuestra lucha por la sostenibilidad

y en esto estamos en cómo nos organizamos para ser proactivos eficaces en la aplicación de la agenda dos mil treinta desde nuestro

comunidad autónoma tanto el grupo nacionalistas vascos como socialistas vascos y elkarrekin podemos han hecho enmiendas todas las enmiendas eran en la misma dirección con el ánimo de contribuir a establecer unos mecanismos para la aplicación de estas acciones en nuestra comunidad autónoma

propuesta de enmienda de transacción que es la que les voy a hacer referencia y es a lo que nos comprometemos esta cámara

presente en el plazo de un año la estrategia vasca de desarrollo sostenible dos mil veinte dos mil treinta para el país vasco que integre los objetivos y las metas de la agenda internacional de desarrollo sostenible dos mil treinta con un enfoque trasversal a todas la políticas públicas

elabore un informe de sus respectivas políticas públicas contrastadas con la agenda dos mil treinta y presente en el plazo de seis meses

el grado de cumplimiento en el que se encuentra cada objetivo lo que venimos a decir en otras ocasiones un diagnóstico de la realidad contrastado con lo que laque la agenda dos mil treinta nos compromete o nos exige

autonómicas nacionales y del grupo de alto nivel para la agenda dos mil treinta con el propósito de conseguir una mayor eficacia en la implantación de los objetivo

también el gobierno de españa ha nombrado un responsable esto es bueno porque hace falta una referencia que lidere este trabajo

así como su presentación en el foro político de alto nivel que se desarrollará todos los años en julio en nueva york en el punto quinto

colaboren entre ellas y con el tejido social en la difusión sensibilización e implantación de la agenda dos mil treinta esta agenda es una agenda que

integre en la sociedad y que todos seamos proactivos en su aplicación

de las políticas o de los objetivos que están dentro de esta agenda también en punto seis instamos al gobierno vasco a que junto con el resto de las instituciones implicadas y en base a los informes de evaluación

a las necesidades precisas para conseguir los objetivos y las metas de la agenda dos mil treinta incrementando aquellas partidas que sean necesarias en los próximos ejercicios

instamos al parlamento vasco nos comprometamos a crear un intergupo para el seguimiento de agenda dos mil treinta

que permita la participación parlamentaria en los foros pertinentes lo que hemos resumiendo dicho en esta enmienda de transacción es qué nos comprometemos a hacer que lo vamos a divulgar y que además lo vamos a evaluar

trabajamos todos en esta línea el resultado de esta comunidad autónoma puede ser muy positivo para el resto de españa y la comunidad nada más muchas gracias

los violentos lo patean como si fuera una pelota juegan con él los señores de la guerra como si fuera una granada de mano y los voraces lo exprimen como si fuera un limón a esta paso me temo

más que una piedra muerta girando en el espacio sin tierra sin agua sin aire

de eso se trata señor futuro yo le pido nosotras le pedimos que no se deje desalojar para estar para ser necesitamos que usted siga que usted siga siendo que usted nos ayude a defender su casa que es la casa del tiempo creo que no hay mejor resumen que estas palabras de galdeano para explicar lo que supone el reto de los ods de la agenda

treinta el reto del futuro del futuro del planeta y de las personas estamos ante una agenda ya les he explicado que nace después de la revisión de los objetivos

que en líneas generales fueron un fracaso una agenda que nace

una apuesta por la transformación pero

de acuerdos y parafraseando al pepe pepe mujica hay que saludar el esfuerzo hecho pero no sin señalar que la causa del problema no es la crisis del medioambiente

sino que es el modelo de civilización que nos hemos montado es decir si no hay cambios de raíz no hay soluciones efectivas para la transformación

begi bistakoa da la semana

a la presentación de la agenda vasca dos mil treinta y al ojearlo este documento experimentamos una especie

un poco al inicio de legislatura y la verdad que cuando nos pusimos a ojear y estuvimos mirando los distintos objetivos y propuestas que hacia

nos dimos cuenta que no era más que un encaje un refrito del programa de gobierno en la agenda dos mil treinta es verdad y tengo que reconocerlo que es un refrito rico con condimento bien presentado

en definitiva y al fin y al cabo un refrito claro que hay avances y claro que el programa de gobierno estoy seguro que supondrá avances en algunas de las metas que supone

más inclusiva más transformadora de la agenda veinte yo creo que en aquella presentación además se vio algo muy claro y creo que las palabras más sinceras fueron por parte del representante de la patronal

dijo que era un documento la agenda dos mil treinta y la adaptación

una agenda para maquillar para perfilar

del capitalismo el único modelo en el que se busca aplicar

esta agenda y si renunciamos por tanto en esas palabras tan sinceras por parte de la patronal

con unos cambios con chapa y pintura pero con el mismo al mando porque sin cuestionar sin hacer los cambios estructurales que tan necesarios son para acabar con las desigualdades sin cuestionar las relaciones de poder

estructurales y en el documento como decía es imposible ahora en diez minutos comentar la agenda completa

de los objetivos que se plantea de las metas que se plantea el gobierno

la meta dos habla de garantizar la adecuada utilización de las ayudas sociales para que lleguen a las personas que más lo necesitan impulsando la colaboración entre instituciones y la interconexión

titular garantizar el derecho subjetivo a la garantía de ingresos a través de una reforma inclusiva y garantista de la misma yo creo que se podría

seguir llamando ayudas a las prestaciones sociales que son reconocidos por ley yo creo que mínimamente es

cuestionable y más si lo comparamos todavía con el objetivo dieciséis sobre transparencia buen gobierno en la lucha contra la corrupción el indicador que vemos en la agenda vasca es la opinión sobre el funcionamiento democrático del país

y encuestas para las situaciones de corrupción yo creo que son dos varas de medir que no podemos

por no comparar por ejemplo lo que dice sobre la pobreza energética más allá de las ayuda de emergencia social el gobierno vasco sigue incumpliendo un mandato parlamentario sobre el indicador del consumidor

haciendo análisis del análisis del estudio del análisis como la respuesta que me dio el consejero de vivienda sigue sin cumplir un año después el mandato

a la materia de igualdad una materia donde ya se ha dicho por parte de mis compañeras donde el gobierno sigue con un piloto automático puesto con un movimiento feminista vasco plural que ha adelantado de manera contundente a las instituciones y que exige una agenda feminista del dos mil dieciocho y no de los años

aunque también la falta de transformación de la agenda no se demuestra solo en casa se demuestra también en lo que hacemos fuera

para el desarrollo hasta ahí palabras textuales de la agenda pero creo que quedarse de brazos cruzados y estamos hablando y lo vuelvo a decir de emitir una declaración política de una declaración del gobierno de quedarse de brazos cruzados mientras que el puerto de bilbao para la venta de armas a países que vulneran los derechos humanos creo que no es ningún método alternativo para ayudar a resolver conflictos ni supone ninguna cooperación al desarrollo insisto una declaración del gobierno como hay gobiernos muy cercanos al nuestro

hecho o hablar del marco de referencia para la coherencia de políticas para el desarrollo como instrumento de planificación complementario a la estrategia de internacionalización que fue presentado en recientes semanas creo que no es nada coherente

ya ha sido suficientemente analizado y criticado por la parte social por la coordinadora de ong y por tantas y tantas personas que

que es un plan que no tiene en cuenta más allá de los intereses económicos de las empresas vascas y que obvia y eso lo dice el propio informe de la coordinadora que obvia e incluso contradice el desarrollo sostenible uno de los elementos fundamentales de la agenda treinta ekimena

a la acción exterior del gobierno vasco y al marco de coherencia de políticas por ejemplo baina egia da zazpigarren puntuan legebiltzar honek agenda hau jorratzeko

eta abar porque inter grupos sin participación como decía el señor egibar son paisajes

con un amplio acuerdo en la agenda que debería centrar nuestros esfuerzos la agenda del desarrollo sostenible de la igualdad

de la vida de la erradicación de la pobreza y la exclusión de la generación de oportunidades para el conjunto de la ciudadanía

una agenda que está en el proyecto socialista que se incorporó al acuerdo de gobernabilidad y que hoy ratifica el parlamento por eso ha sido fácil alcanzar

aprobaron la agenda dos mil treinta más de ciento cincuenta países a través de sus jefes de estado de gobierno en la cumbre del desarrollo

dentro de la misma se recogen diecinueve objetivos de desarrollo sostenible

por naciones unidas para el dos mil treinta que constituyen un verdadero reto mundial para conseguir el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza en todas sus formas el porcentaje de personas con nutrición insuficiente y la tasa

en desarrollo en el mundo erradicar la pobreza es la base del desarrollo sostenible afectando áreas muy diversas como pueden ser los ingresos

a los servicios básicos así como contar con sistemas de protección adecuados que ayuden a prevenir y reducir la pobreza y la desigualdad en las diferentes etapas de la vida

la pobreza y promover la prosperidad sin alcanzar a los grupos más vulnerables tampoco olvida el área de los compromisos ambientales y en ello aborda la degradación de los océanos que supone una amenaza en la lucha para la erradicación

aspecto relevante dentro de la misma es la integración de los temas ambientales y del cambio climático y la adopción del concepto del desarrollo sostenible como eje articulador de la agencia dos mil treinta y los objetivos de desarrollo

la pobreza confluyentes en los objetivos del desarrollo del milenio con la agencia ambiental que se deriva de la cumbre de rio abarca en otro

relacionados con el buen gobierno y la promoción de la convivencia pacífica dado que el desarrollo sostenible depende de defender los derechos humanos

y la seguridad y por otra parte destaca la importancia que tienen dentro de la nueva agenda los temas de igualdad de género

y ampliándose con la eliminación de la violencia de género y la erradicación de prácticas como el matrimonio infantil o forzado

como lo vemos en el lento progreso seguido en la representación de la mujer en la política y también lo vemos en la violencia de género se necesita un progreso más categórico en aspectos como la energía sostenibles infraestructuras sostenibles entre otros además el progreso ha sido desigual no solo en las diferentes regiones también entre

también según la edad de las personas su riqueza y el lugar donde viven pero para poder conseguir sus objetivos

por todos los países y sus diferentes gobiernos y dentro del informe elaborado en dos mil diecisiete sobre los objetivos de desarrollo sostenible

se destaca que el ritmo de progreso en muchas áreas incluidas dentro de la misma está siendo más lento de lo necesario para poder alcanzar dichos objetivos para el año dos mil treinta tenemos que marcarnos objetivos sin perder el tiempo si queremos cumplir todos ellos debiendo de ser el progreso

también es de extrema importancia la necesidad de contar con datos fiables accesibles

para poder medir este progreso la falta de evidencia rigurosa de datos

para poder documentar de una forma más precisa las discriminaciones que sufren diferentes colectivos que puede afectar a la planificación y presupuestación de servicios necesarios y a la elaboración de las normas necesarias

por eso creo que la enmienda transaccional que hemos acordado por los grupos nacionalista vasco mi grupo los socialistas vascos y el grupo popular tiene una gran importancia para caminar en la línea indicada para poder conseguir los objetivos marcados en la agencia

y en la estrategia de desarrollo sostenible aportando nuestro esfuerzo también y nuestro granito de arena desde las instituciones de nuestra comunidad autónoma y dentro de esta enmienda transaccional se hace referencia

a que se insta por parte del parlamento al gobierno vasco para que en el plazo de un año se elabore de su estrategia

vasca de desarrollo sostenible dos mil veinte dos mil treinta para el país vasco donde se recogerá los objetivos y metas

transversal para todas las políticas públicas y todas las instituciones vascas también en segundo lugar se le insta

en seis meses un documento que se recojan en qué grados de cumplimientos están

de esos objetivos y también decidir cuál será el órgano o ente que tenga coordinar esas políticas locales forales autonómicas nacionales y del grupo del alto nivel para la agencia dos mil treinta por otra parte también

se le insta al gobierno vasco y a otras instituciones a que colaboren

así como su presentación dentro del foro político de alto nivel que se celebran en julio

y luego también a colaborar en la difusión sensibilización implicación de la agencia dos mil treinta

seguimiento pues adaptar las estructuras presupuestarias para poder conseguir dichos objetivos y es importante en el punto

un inter grupo para el seguimiento de esa agencia europea por ello nosotros votaremos a favor de la enmienda transaccional firmada por los tres grupos nacionalistas vascos socialistas y el grupo popular y

señor martínez que por parte del grupo elkarrekin podemos solo quieran votar en determinados puntos pero no entiendo qué problema pueden tener para su votación otros puntos que se recogen dentro

transaccional en la que lo que se está pidiendo es cuestiones tan importantes como determinar qué órganos será el encargado de toda esa coordinación o se recoge también la necesidad de hacer hincapié en esa difusión sensibilización

dos mil treinta o también hacer referencia a la necesidad de adaptar los presupuestos para

no entiendo qué problema pueden tener esos puntos para que no puedan ser votados por su grupo porque yo creo que son complementarios

de todo lo que se está pidiendo y facilitan mucho más pues el cumplimiento de estos objetivos y
sin más pues nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea

bai mahaiburu andrea lehendakari legebiltzarkideok arratsalde on guztioi la carta de las naciones unidas comienza con la célebre frase nosotros los pueblos

en nuestro viaje nos acompañarán los gobiernos así como los parlamentos el sistema de naciones unidas y otras instituciones internacionales las autoridades locales

la sociedad civil las empresas el sector privado la comunidad científica y académica y toda la población ya se han comprometido con esta agenda

que la asumirán como propia es una agenda del pueblo por el pueblo y para el pueblo y precisamente por ello creemos que tiene el éxito garantizado así reza

de la agenda dos mil treinta para el desarrollo sostenible que también se llama transformar nuestro mundo me voy a retrotraer a mil novecientos ochenta y siete cuando la comisión mundial de medioambiente y desarrollo de naciones unidas

aprobó y publicó el informe nuestro futuro común

como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades este informe fue la base de las discusiones que a partir de ahí dieron paso a todo un desarrollo de la idea

en todo el mundo no voy a citarles todo solamente alguna referencia puntual en mil novecientos noventa y dos la cumbre de la tierra la conferencia río noventa y dos con su declaración de ríos sobre medioambiente y desarrollo en mil novecientos noventa y cuatro la carta de aalborg

donde se establecieron los modelos de agendas veintiuno urbanas por cierto quiero compartir con ustedes que vitoria gasteiz una de nuestras ciudades fue la primera ciudad del estado en firmar la carta de aalborg en mil novecientos noventa y cinco

en el año dos mil como también se ha citado aquí los objetivos de desarrollo del milenio pero a la par que en el plan internacional se iban desarrollando todo este marco de referencia

y también sin ánimo de ser exhaustiva citaré solo algunos ejemplos en dos mil uno el lehendakari ibarretxe adoptó el compromiso por la sostenibilidad del país vasco en dos mil dos el consejo de gobierno aprobó la estrategia vasca de desarrollo sostenible dos mil dos dos mil veinte todavía vigente

dos mil dos coincidiendo con el día mundial del medioambiente y además lo hacía en desarrollo de la ley general del medioambiente del noventa y ocho también en el mismo momento se aprobó

y sucesivamente y en los momentos que correspondía el gobierno vasco ha ido aprobando todos los programas marcos necesarios cada cuatro años hasta el actualmente vigente

también el programa de agenda escolar veintiuno de educación por la sostenibilidad con el setenta por ciento de centros de enseñanza obligatoria de euskadi

trabajando en estos programas un veinte por ciento de estas escuelas que están en estos programas de sostenibilidad certificadas como escuelas sostenibles y reconocidas así por la unesco

de euskadi fuimos reconocidos en el dos mil catorce en japón por la unesco en la ciudad de nagoya

de la década en todo el mundo y cómo olvidar el programa udal sarea también reconocido como buena práctica para la localización de la agenda

bajo la coordinación del gobierno vasco con la secretaría del gobierno vasco ciento ochenta y tres municipios trabajando por la sostenibilidad en sus agendas veintiuno el departamento de salud las diputaciones forales el ebe el departamento de medioambiente ura y un sistema de evaluación de políticas

y con este bagaje llegamos a un nuevo marco

como ya se ha dicho aquí en dos mil quince tenemos un año clave

también el acuerdo de parís del cambio climático que de alguna manera luego también se engloba

que como bien a dicho la señora lópez de ocariz hablamos de un mundo de ciudades de un planeta de ciudades creo que los tres elementos la agenda dos mil treinta el acuerdo de parís y la agenda urbana de quito

en todos ellos en la definición de este nuevo marco estuvo presente euskadi estuvo presente euskadi a través de las redes en las que trabaja de las redes internacionales en las que trabaja y cuando digo euskadi no me refiero solo al gobierno y a las instituciones que por supuesto lideraban este proceso

y ese es el mayor valor que yo encuentro en la red de sostenibilidad que hemos sabido crear entre todos en euskadi tampoco quiero aburrirles con citar

a udalsarea de nuevo ayuntamientos grandes y pequeños los de las capitales legazpi amurrio durango

quiero reconocer aquí el trabajo de tantas personas en euskadi luchando desde hace

por la sostenibilidad y euskadi sigue avanzando sigue avanzando y a partir de esa aprobación de ese nuevo marco que yo le llamo tenemos más aprobaciones tenemos aprobado el marco de coherencia de políticas para el desarrollo

la nueva estrategia de educación para la transformación social abian en dos mil diecisiete

que se celebró también en euskadi con todo esto quiero decirles que euskadi ha sido y es un ejemplo y un referente en sostenibilidad en el mundo

caballo perro no es un auténtico binomio fantástico es una simple asociación

la imagen asiste indiferente a la evocación de los dos cuadrúpedos

excitante es necesaria una cierta distancia entre las dos palabras que una sea suficientemente a la otra y su unión discretamente insólita para que la imaginación se ponga en movimiento buscándoles un parentesco una situación fantástica en que los dos elementos extraños puedan convivir eso nos ha paso con los conceptos de partido popular y objetivos de desarrollo sostenible

tan dispares que hemos tenido que poner a volar nuestra imaginación porque en la realidad muchas de las políticas que se está implementando desde el gobierno de rajoy van en el sentido totalmente opuesto lo suyo son objetivos de desarrollo

y aquí queremos hablar de vidas sostenibles vidas que merezcan la pena ser vividas continúa rodari la historia en este punto es solo materia prima trabajarla hasta el producto acabado sería el trabajo

seamos nosotras pues las escritoras hagamos aquí trabajo fantástico que nos propone rodari y por ello es de agradecer que aunque nos haya sorprendido sea el partido popular quien traiga esta iniciativa a la cámara dice rodari que el disparate debe permanecer como tal esto es una técnica que los niños llegan a dominar con facilidad poca diversión el ejercicio bien entendido tiene una gran importancia sin olvidar la alegría que nos proporciona en nuestras escuelas dice él y yo le incorporo en nuestros parlamentos se ríe demasiado poco pues eso os propongo

que da la creación el trabajo de la fantasía nos riamos disfrutemos pero que nos pongamos

de manera seria pero feliz porque la felicidad que proporciona saber que se puede hacer algo

por la felicidad que tenemos como objetivo para todas las personas que habitan este planeta azaldu da dagoeneko mundu mailako agintariek aho batez

y disponer de instrumentos de resolución de conflictos entre políticas diferentes cuando se den contradicciones entre ellas en torno al respeto de los derechos humanos o al desarrollo sostenible tanto a nivel doméstico como en terceros países venta de armas paraísos fiscales degradación medioambiental comercio

a que soñemos con lo imposible y andemos ese camino fantástico soñemos y conspiremos

por todas y todos y por este planeta como canta doctor deseo el placer de conspirar poner el mundo al revés como dos niños traviesos
es el momento de asaltar el paraíso eskerrik asko etxebarrieta

este punto del orden del día de hoy del pleno

su página para divulgar los objetivos de desarrollo sostenible y que seguramente va a ser parte importante en la divulgación y en los trabajos que esta comunidad autónoma dedique a la gestión de la agenda dos mil treinta señor martínez le entiendo perfectamente los matices que usted ha puesto aquí sobre la mesa pero sé

tanto su grupo también en las alianzas trasversales que requiere

de toda la sociedad en la puesta en marcha de estos objetivos y señora etxebarrieta existe el diferente no es un cuento es una realidad

es no dejar a nadie aislado implicar al cien por ciento de la sociedad y a todos los países también al diferente eskerrik asko

preguntaba la señora sánchez que por qué pues el uno el dos y el siete porque son temas que se van a hacer y el resto de los temas es que están aquí puesto lo tengo hasta

exterior el informe de seguimiento anual también está aquí la coordinación interinstitucional también la comisión interinstitucional de acción exterior el presupuesto que se adapte también está aquí pero se adaptan las partidas presupuestarias y lo que hay que hacer es adaptar las políticas también lo que es la parte teórica de las políticas a la agenda

al programa de gobierno por eso somos críticos y por eso

nos vamos a abstener y a la señora

en euskadi pero seguimos necesitando el último informe sino recuerdo mal es de hace más de diez años dos euskadi y medidas para

que tiene euskadi beraz

transaccional y que nosotros seguimos creyendo que todos los puntos de esta enmienda transaccional son importantes
porque son complementarios unos y otros nada más muchas gracias eskerrik asko sánchez anderea

su comentario si no me falla la memoria que no me suele fallar era que todo

mal utilizar para maquillar pero no era el caso y que precisamente estaban en una voluntad de trabajo leal con la agenda

de toda su organización también

lo que hace es plasmar como nos había prometido el lehendakari que iba a hacer el gobierno

en la presentación del plan de gobierno plasmar o aunar alinear los planes las propuestas de ley alinearlas con los objetivos de desarrollo sostenible ese es un paso que hay que dar

y medir hay que seguir haciendo y estoy segura que el gobierno va a seguir trabajando

y en qué cuestiones vamos avanzando en cuáles no cuáles hay que cambiar cuáles hay que corregir y cuáles hay que fortalecer porque como he dicho antes el recorrido en sostenibilidad de euskadi es largo y completo desde hace ya décadas eta

beraz ikusi behar dugu qué efectos tienen la actividad económica

y los servicios ambientales en la economía y los servicios ambientales en la sociedad y la sociedad en el medioambiente y las variables sociales en la economía es decir que tenemos que cruzar todo con todo

la agenda dos mil treinta y esto es lo que pretenden o lo que tenemos encima de la mesa desde hace muchos años con las políticas de sostenibilidad y para terminar por mi parte también

un libro que acababa de salir estuve esperando a que saliera además que se llama

que ha publicado como digo el verano pasado y donde ella un espacio seguro y justo para la humanidad marca un suelo social que son los derechos humanos universales y un techo que son los límites ecológicos del planeta
que estaba en castellano en las novedades de nuestra biblioteca si no lo han leído se lo recomiendo en castellano es la economía rosquilla eskerrik asko eskerrik asko

ciudadanas de más de dieciséis años en aho bizi y belarri prest

son personas que hablan en euskera a todas las personas que lo entienden por su parte belarri prest son quienes entendiendo el euskera invitan al resto

aunque la iniciativa se desarrollará en todo el país vasco serán euskaltzales de cada lugar quienes impulsarán las dinámicas de cada municipio y será adaptable a la realidad y contexto sociolingüístico

por tanto participarán en la organización grupos de euskaltzales de diferentes comarcas municipios y barrios así como diferentes asociaciones empresas e instituciones